el marco internacional común para las organizaciones deportivas que la agencia mundial antidopaje había elaborado en dos mil tres

era la referencia ineludible para las instituciones públicas implicadas en la lucha contra el dopaje bi mila hiruko kodea hark hainbat aldaketa izan ditu gerora

como consecuencia de ello en dos mil dieciséis el gobierno vasco remitió un nuevo proyecto de ley al parlamento en el que incluyó las modificaciones que se derivaban del nuevo código mundial

no permitió su aprobación el calendario legislativo elaborado por el gobierno vasco para la presente legislatura recoge el proyecto ha decaído y ha sido hoy aprobado por el gobierno vasco

es el que hemos presentado al parlamento para su debate y aprobación paso a comentar las principales novedades que el texto incorpora en primer lugar el texto aprobado reconoce a la agencia vasca antidopaje como el servicio especializado

en total la modificación de ley que presentamos afecta a diecinueve artículos de la ley del dos mil doce e

por último en relación al doping animal me gustaría resaltar que la actual ley contra el dopaje regula toda una serie de aspectos que afectan de forma específica

alterados por la modificación que hoy presentamos es más a mayor abundamiento tanto de la ley del dos mil doce contra el dopaje como de las propias actuaciones llevadas a cabo por las autoridades antidopaje y protección del bienestar animal

todos ellos demuestran un firme compromiso en todo lo relativo a dicha materia o campo la ley del dos mil doce contra el dopaje tiene previstos un desarrollo de dicha disposición normativa para regular de forma pormenorizada o específica las cuestiones que de forma particular

precisamente sobre dicha regulación de desarrollo por parte de la agencia vasca antidopaje ya se está trabajando en colaboración tanto con las federaciones deportivas afectadas como con el resto de autoridades con competencia en ganadería es importante apuntar que la protección del bienestar animal en las competiciones deportivas con animales

ya se vienen llevando a cabo a través de las actuaciones llevadas a cabo por parte de las autoridades competentes de los territorios históricos con competencia

de esta forma la agencia vasca antidopaje y las federaciones deportivas están trabajando en materia de control de dopaje en competiciones donde intervienen animales con el fin de establecer un marco regulador

la ley que presentamos por tanto se adapta a las necesidades reales del deporte y sigue el mismo esquema que las disposiciones normativas de otros ámbitos abunda en los aspectos más importantes en la materia y conjuga las previsiones del referido código mundial

y el del marco legal del país vasco en relación con el deporte incluye también un régimen especial de infracciones o sanciones que es uno de los aspectos o cuestiones donde la armonización u homogeneización resulta del todo necesaria confío en que el proyecto que presentamos cuente

egun on lehendakari jauna buenos días a todas las parlamentarias

presentado por la dirección de actividad física y deporte desde elkarrekin podemos así lo hemos expresado en nuestras intervenciones durante el proceso de las comparecencias y el debate en la comisión queremos recalcar la importancia de este documento y lo necesaria que nos parece la revisión

de esta manera valoramos muy positivamente la adaptación y la actualización de esta institución al marco internacional y al código mundial antidopaje

por diferentes agentes del sector deportivo desde hace tiempo en opinión de nuestro grupo deja puntos clave sin desarrollar y sin adaptarse íntegra y completa a las necesidades reales que supone la lucha contra el dopaje en el deporte en todos sus ámbitos y disciplinas para elkarrekin podemos este proyecto adolece de algunas carencias que vamos a tratar de enumerar a continuación y que nos gustaría que se tuvieran en cuenta para que entre todas elaboremos una ley acorde a los nuevos tiempos y necesidades del deporte en euskadi en primer el desarrollo por ley del pasaporte biológico

es bajo nuestro punto de vista un elemento integral dentro de las estrategias innovadoras en la lucha contra el dopaje que serviría para aumentar la seguridad y la salud de nuestros deportistas desde una temprana edad hasta las categorías senior o profesionales el mundo del deporte y el antidopaje continúa evolucionando al enfrentarse a desafíos crecientes

en las últimas décadas encontrándose estas sustancias ahora fácilmente

hay sustancias nuevas que son más difíciles de detectar su potencial para proporcionar un beneficio económico significativo ha alentado la presencia de sofisticados grupos y redes

los nuevos módulos del pasaporte biológico del deportista para poder detectar e impedir el dopaje

también nos parece fundamental la creación y difusión de programas antidopaje claros cuyo contenido busque la concienciación ciudadana en todos los niveles las diversas prácticas de dopaje

de los principios fundamentales de la ética deportiva hoy en día el dopaje ha superado el ámbito de la ética deportiva para convertirse en un problema de salud pública estos

con la participación de todos los entes y agentes del sector

formativas divulgativas de sensibilización así como de prevención en materia de salud y dopaje una de las carencias más significativas que hemos encontrado en esta modificación del proyecto es la ausencia de referencias a un apartado claro y definido

este tipo de doping también es deplorable y debe estar perseguido y contemplado en esta ley es una evidencia y una realidad que también hay que contemplar la presencia de sustancias dopantes en organismos animales

nació para referirse a animales fue registrada por primera vez en mil ochocientos ochenta y nueve para denominar una mezcla de opio y narcóticos

de hecho los primeros controles antidopaje no fueron con humanos sino realizados a cuadrúpedos que participaban en carreras y competiciones en mil novecientos diez

propias se han contaminado hasta el punto de que los propios ganaderos sospechan entre sí

ha disminuido notablemente el mercado de apuestas una prueba concluyente de le generalización de los amaños ha habido varios bueyes y caballos fallecidos en diversas localidades vascas en los últimos tres años no podemos mirar para otro lado ante esta realidad

ex presidente de federación vasca de herri kirolak abandonó el cargo en dos mil dieciséis ante la impotencia en su lucha contra el dopaje

en estas devaluadas pruebas rurales ureta declaró en diversas ocasiones

dejándolo todo a las federaciones que cito textualmente son un círculo perverso que no tienen recursos para encargarse de su tramitación e instrucción la situación empeoró tanto que parece haber llamado la atención por fin del gobierno vasco este año se han abierto varias investigaciones sobre conductas irregulares con animales de competición la costumbre de abusar de animales

si desde las instituciones afrontamos por fin el problema con una ley específica o con un apartado concreto y detallado que se incluya en esta modificación de ley

respetando y considerando siempre la ley de protección de datos además tal y como contempla la propuesta presentada por el gobierno se debería negar cualquier subvención o ayuda

que hayan sido sancionados por infringir la normativa antidopaje o que rehúsen a someterse a los controles correspondientes

se debería además reclamar también cualquier ayuda pública recibida en el texto que se nos ha presentado una de las modificaciones más importantes

de manera que en los casos en los que la infracción está relacionada con una sustancia específica cuyo objetivo no sea tratar un problema sino estrictamente mejorar el rendimiento deportivo

las sanciones aumentarán de dos a cuatro años sin embargo para nosotras también sería necesario introducir cambios en las sanciones económicas a deportistas clubs

por último queremos señalar que en la lucha contra el dopaje son fundamentales las medidas de prevención y para ponerlas en práctica

y una asignación anual para el desarrollo de estas medidas relacionadas con la prevención la investigación y el desarrollo de nuevas actividades preventivas contra el dopaje en todos los niveles deportivos

de la agencia vasca antidopaje como el órgano competente para desarrollar las labores en materia de lucha contra el dopaje es una de las aportaciones fundamentales del nuevo documento y que valoramos de forma

por todo lo anteriormente expuesto y dejando muy clara toda nuestra disposición a colaborar presentamos una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de modificación contra el dopaje en el deporte en euskadi para nosotras uno de los objetivos fundamentales de la lucha antidopaje pasa por garantizar que la futura generación de deportistas

y compita en igualdad de condiciones para ello es imprescindible

enviemos un mensaje potente cuando el gobierno y el deporte coordinan sus esfuerzos la lucha contra

este planteamiento armonizado y colaborador entre dichas dos fuerzas en la lucha contra el dopaje es la razón fundamental que subyace al código mundial antidopaje

del que creemos que hay que partir para poner en marcha el documento que hoy nos presenta desde elkarrekin podemos valoramos que la propuesta normativa del gobierno vasco es insuficiente

tenemos que ser innovadores y contundentes en la lucha contra el dopaje si queremos que el deporte y la actividad física sean parte de la vida diaria de todas las personas que viven en euskadi

integrador inclusivo y ético con nosotras mismas y con los animales entre las personas más jóvenes de nuestra sociedad la igualdad de condiciones es fundamental en la formación y en el desarrollo de las diferentes competiciones el mundo del deporte de ha visto salpicado en los últimos tiempos por varios escándalos que ponen de manifiesto

ante los ojos de los aficionados y aficionadas el dopaje es uno de ellos desde las instituciones organismos responsables y gobiernos

una mayor labor de prevención y vigilancia nuevas normativas más restrictivas y sanciones más duras entre todas y desde la coordinación tenemos que buscar las medidas para hacer frente a unas actividades que mueven miles de millónes en todo el mundo hay que ver

a costa de la salud de los y las deportistas pero esto ya es otra cuestión mila esker eskerrik asko garcía

bien nosotros no compartimos la oportunidad de una devolución de este proyecto de ley al gobierno entendemos que el proyecto

seguramente perfectible no nos cabe ninguna duda

objetivas para manifestar una oposición a este documento parlamentario

nosotros desde luego eso pretendemos con nuestras enmiendas parciales además

el discurso porque el discurso es de necesidad el que ha hecho usted del proyecto de ley

que no haya enmiendas parciales por su parte sí que había una enmienda de totalidad un poco maximalista en relación con el proyecto de ley

se completa con enmiendas parciales que sustentan precisamente los argumentos que usted nos ha trasladado aquí a la cámara en relación con desarrollar o mejorar o perfeccionar

yo creo que sus planteamientos están además de una u otra manera

de una u otra manera incluidos en normativas en esta normativa probablemente

pero sí que es posible que pueda haber alguna posibilidad de mejora nosotros eso vamos a tratar de hacer en el trámite de ponencia en relación con este texto esa posibilidad de mejora desde luego no justifica desde nuestro punto de vista una enmienda de totalidad

en absoluto creo que no es procedente una enmienda de totalidad no es procedente devolver el texto al gobierno es

sobre el mismo y sí tramitar desde luego definitivamente porque es necesaria

de lo que es el código mundial antidopaje aquel congreso de johannesburgo y

nosotros entendemos que eso es así no se pudo hacer como ha recordado el consejero al final de la pasada legislatura que estaba prácticamente la posibilidad esa se acabó la legislatura y desde luego tenemos que retomar

haber oído a los expertos en relación con esta cuestión

que reformar ese tema esa cuestión la ley del dopaje vasca en la medida que se pudiera hacer por ello entendemos necesario nosotros como grupo parlamentario trabajar en ponencia

de un deporte que todos queremos un deporte sin trampas un deporte sin doping

además como he dicho al principio usted señora garcía ha reconocido la necesidad

habla de carencias pero no las concreta en enmiendas parciales que hubiese sido quizá interesantes

el discurso que usted ha hecho no es un discurso de oposición es un discurso

nos sorprende es decir las cuestiones de las que usted ha hablado porque además se dejan puntos sin desarrollar es decir pues se podrían haber desarrollado con la aportación que

entendemos que aquí hay una cuestión que también no tiene que ver con esta adecuación que pide el código mundial

tiene que ver con la actuación de muchos factores el del gobierno vasco de las diputaciones forales en relación con la neutralización de esas trampas en el deporte rural

hay planteamientos distintos o discrepantes en relación con los registros que usted plantea

para poderlo debatir o para poder hacer un análisis y desde luego la aportación de presupuesto

de un documento legislativo forma parte de la actividad normal del ejecutivo a la que se le puede exigir a través de los presupuestos

hay un planteamiento de oposición que nosotros no entendemos muy bien
señora garcía votaremos en contra de su enmienda de totalidad muchas gracias eskerrik asko

la manifestada con respecto al proyecto ley ya lo hicimos en la comparecencia que efectuó el consejero dentro de la comisión

del mismo y respecto a la enmienda de totalidad algunos de los argumentos han sido ya citados por el señor barrio que con el mayor de los respetos entendemos de verdad que a

de la enmienda de totalidad y más después de escuchar

la proponente y la que mantiene la enmienda de totalidad hace una valoración positiva no solo de la necesidad sino de la oportunidad de modificación de la ley del dos mil doce habida cuenta

y yo creía que la oportunidad estaba compartida también respecto a estos aspectos que se señalan que se citan someramente en la enmienda de totalidad se podían haber presentado

parlamentarios además sobre algunos de los aspectos citados en la enmienda de totalidad y podríamos haber trabajado de verdad en la ponencia yo creo un texto mucho más amplio en el consenso político que ya existe

dado además las explicaciones que se han dado

antidopaje y el régimen de sanciones además dentro de estos temas

no entendemos la enmienda de totalidad y por eso como nosotros no queremos devolver un proyecto con tan amplio consenso político e institucional vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad eso sí

que los grupos parlamentarios han presentado vía enmienda parcial para como

mucho más amplio respecto a algunas de las cuestiones planteadas además es que ya están previstas en la ley que modifica lo ha dicho el consejero

animal y alguna otra cuestión pero con respecto al pasaporte biológico además

un instrumento a nivel internacional pero que no nos podemos resistir a eso porque en esta materia las investigaciones y la tecnología cada vez

contra el dopaje por lo tanto creo de verdad en su disposición

mediante enmiendas parciales todas esas aportaciones no dejar de decir que le invito a trabajar en la ponencia aunque sea a través de las enmiendas parciales presentadas por otros grupos parlamentarios eh bildu y el partido popular porque algunas de estas cuestiones también están tratadas porque yo creo que efectivamente ningún grupo político de la cámara

de una ley no sé si ahí va a haber muchas como estas en el parlamento

consenso en los contenidos y en la necesidad de aprobarla muchas gracias

ekimena aurkeztu eta defendatzeko gracias presidenta buenos días de nuevo consejeros

es amplio esta moción es consecuencia de la interpelación que sobre medicina de precisión planteamos el pasado pleno

y en el que pudimos ver la oportunidad de dar eso que pretendíamos un impulso a lo que ya es una necesidad de futuro en el cuidado de la salud

a todos los niveles sí que es cierto que hemos conseguido un amplio acuerdo al que en breve me referiré y que en cada ámbito gubernamental y en cada sistema de decisión sanitaria

imparable el impulso total pero coordinado también y estratégico en relación con la implantación de la llamada medicina de precisión

medicina genómica el desarrollo de esta forma de medicina

fundamentalmente además como lo ha sido hasta ahora de los teóricos o de los investigadores o de las

de los gobiernos que gestionan sistemas públicos de salud como es el nuestro y desde luego su evolución

y en la medicina recientemente además hemos ido leyendo en los medios de comunicación especializados distintas noticias relativas al desarrollo de esa dimensión de la medicina quizás noticias que no salen tanto en los medios

pero sí en determinados medios especializados en relación con el desarrollo y con esta nueva dimensión de la medicina y además hemos visto que se instala un debate político en el desarrollo político de las principales instituciones

para la ponencia en medicina de precisión también lo hacen iniciativas importantes en el congreso de los diputados

auguran expertos que en cinco años este tipo de terapias personalizadas se emplearán en enfermedades crónicas también la dimensión

amplían estos medios de comunicación especializados también dicen que estamos listos para una estrategia de estado

lo debemos de estar en una estrategia europea una estrategia internacional en relación con esta nueva dimensión de la medicina también dicen

que acogerán las dos cámaras de las cortes y además

están otros posicionamientos recientes posicionamientos algunos de ellos muy relevantes como el de las sociedades científicas de oncología médica de anatomía patológica o de farmacia hospitalaria y sus propuestas claras hechas públicas para el desarrollo de la medicina de precisión en nuestro país

dice que la medicina de precisión está transformando la investigación clínica y biomédica así como la asistencia sanitaria tanto desde un punto de vista conceptual como metodológico ofertando oportunidades extraordinarias para mejorar la salud pública reducir los costes del sistema sanitario

la medicina de precisión que se implantará en cualquier caso

que permita garantizar la calidad técnica la equidad de los ciudadanos en el acceso a las mejores prácticas vulnerando los derechos de los pacientes y profesionales y arriesgando la solvencia del sistema de salud por eso nosotros consideramos fundamental esa estrategia general esa estrategia coordinada

en la pasada interpelación la medicina de precisión

personalización de la medicina sino que también juega un papel importantísimo en la prevención y en los hábitos de vida en este terreno los avances tecnológicos

existe como me he referido antes una serie de propuestas y una propuesta para la creación de una estrategia general una estrategia de estado sobre medicina de precisión por sociedades científicas antes he dicho la de oncología la de anatomía patológica o farmacia hospitalaria hay propuestas de recomendaciones en la puesta en marcha de promoción

es fundamental pues el papel activo de los gobiernos como también

y en la pasada interpelación estábamos de acuerdo en ese sentido el consejero y

por otro lado la creación de un marco de financiación así como la promoción de la investigación y de la innovación son las herramientas fundamentales para potenciar los cambios que permitan al sistema sanitario adaptarse a la medicina de precisión sin que esta suponga un desgaste

y hemos ido viendo cómo se han ido abordando en recientes foros importantes auspiciados por universidades pero otros de otras características como el veinticuatro congreso de derecho sanitario el sexto congreso mundial de ciencias farmacéuticas como han destacado en esos importantes foros el importante papel que juega la incorporación

en la evolución en la propia medicina de precisión

hace dos semanas la genética debería ser un componente debe ser está siendo y se está asumiendo lógicamente

un mejor diagnóstico para miles de enfermedades genéticas consejo genético diagnóstico precoz y prevención en familias evaluación pronóstica para prevenir muerte súbita cáncer que es donde más se está trabajando o ictus

investigación y desarrollo en beneficio de los pacientes y de las nuevas generaciones es decir la medicina de precisión ofrece a los ciudadanos una atención personalizada

preventiva y participativa se habla de los ciudadanos y no de pacientes porque esta medicina se aplica también a las personas sanas con un verdadero valor

en definitiva podemos afirmar que la medicina personalizada está cambiando nuestro mundo nuestra capacidad de entender las enfermedades además de ir ligada a lo que llamamos precisamente el empoderamiento del paciente su protagonismo en este caso del ciudadano también

no existían recursos para realizar un diagnóstico mediante la secuenciación del genoma sin embargo la reducción de los costos en la actualidad gracias a los enormes avances en la tecnología ha permitido que la medicina genómica sea una realidad cada vez más presente

y que la mayoría de los países de nuestro entorno hayan puesto en marcha planes para aplicarla entre los elementos qu ese pueden mejorar sustancialmente con la medicina de precisión lo recordábamos también el otro día destacan el diagnóstico de cualquier enfermedad de base genética diagnóstico molecular en cáncer hereditario y esporádico

evitar toxicidades y predecir la respuesta terapéutica un enorme número de complicaciones en relación con estas cuestiones se producen hoy en día por la utilización de falsos fármacos o incorrectos fármacos para el tratamiento de las patologías la medicina preconcepcional

prenatal la susceptibilidad a enfermedades y a eventos prevenibles es decir por

puede remplazar a cientos de estudios médicos y ayudará en el análisis de la compatibilidad de trasplantes o para el desarrollo de conductas preventivas

de medicina genómica de medicina de precisión de medicina personalizada es extremadamente interesante el documento

personalizada de precisión en ese documento se analizan esa necesidad de cambios objetivamente

experiencias las actuaciones que se están llevando a cabo en comunidades autónomas en europa en países europeos en estados unidos y también bueno pues también hace referencia a la realidad del país vasco con el plan ris tres y con la vinculación al plan europeo

dos mil veinte en relación con temas dirigidos

a una propuesta de transacción efectivamente una propuesta es proactiva es decir sabiendo que hay mimbres sabiendo que se trabaja porque también conocemos personas vinculadas a este tema en nuestros hospitales

que hay que seguir avanzando y ese es el propósito de la enmienda de la propuesta de transacción de la moción inicial y de la transacción que hemos acordado con

enmendantes desde luego instamos al gobierno vasco a que siga trabajando para

de la medicina personalizada de precisión y en ese sentido durante el próximo periodo de sesiones se presentará como ya anunciado el plan

en el cual se identificarán se recogerán las actuaciones a llevar a cabo en relación con la implantación de la medicina de precisión es muy importante

bildu también en su enmienda de totalidad hablaba de un informe entendemos que este es un buen primer paso el plan oncológico de euskadi

más potente desarrollo de la medicina de precisión y desde luego yo creo que por eso ha sido oportuna la enmienda de totalidad y haber entendido que en el plan puede servir como ese informe previo en relación con ese estudio en ese ámbito sirviendo como punto de partida para analizar las opciones existentes al objeto de extender

así mismo que tiene que ver con lo que con ese impulso con esa necesidad de coordinación con esas estrategias entonces se insta al gobierno vasco a que siga participando activamente en las iniciativas y estrategias sobre medicina personalizada que se lleven a cabo tanto en el ámbito estatal

a la práctica clínica de manera ordenada garantizando la calidad la equidad y la sostenibilidad del sistema sanitario algo fundamental es el momento clave actualmente en relación con este desarrollo es un momento clave es un momento que los gobiernos lo están percibiendo en europa en el mundo

se está recorriendo un camino que nosotros con esta moción hemos querido impulsar y apoyar decididamente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

oncológico no solo es útil para diagnosticar la presencia de una patología sino que además es valiosa para identificar los tratamientos que más convienen a cada tipo

eta horrela askoz hobeto ezagutzen eta ulertzen dira kontu asko por lo tanto y si desde la perspectiva de un paciente

a la carta si se nos tratase de manera completamente individualizada aplicando los tratamientos según nuestra respuesta

es más si pudiéramos evitar desarrollar una enfermedad de este tipo o pudiéramos diagnosticarla en su fase más temprana gracias a nuestra predisposición genética

seria económicamente más sostenible para el servicio vasco de salud porque en muchos casos se ahorrarían muchos costes no se trata de ahorrar en el tratamiento se trata invertir en prevención en promoción de la salud y en el diagnóstico

eso es lo sostenible y lo deseable además creemos que de alguna manera esto en algunos casos ya se hace pero si esto es lo que se propone se lo compramos y se lo hemos comprado

y estos avances los logros en el campo de la investigación se pueden aplicar o incluso realizar desde diferentes ámbitos y ahí es precisamente donde radican nuestras dudas o temores adibidez jakin badakigu coalición de medicina personalizada delakoan dauden kideak

pero también es cierto que al parecer y según nos han dicho la aplicación de la medicina de precisión en araba

y que de momento es aplicable únicamente en el área oncológica sin menoscabo de que paulatinamente

en la enmienda de transacción se habla precisamente de eso de presentar en este parlamento las líneas de actuación para implantar la medicina de precisión pero dentro

integral de euskadi tenemos herramientas contamos con investigadores e investigadoras que realizan un trabajo muy valioso y referente en muchos casos hay recursos públicos suficientes para ir abordando la medicina de precisión poco a poco igual más lento pero será mejor y este no nos parece un mal punto de partida por eso

pero eso sí con nuestras reservas y confiando en que esta vez el departamento nos presente un plan eficaz ampliamente acordado y contrastado

desde lo público porque ese planteamiento diferiría bastante del último plan que el departamento de salud nos ha presentado por eso décimos que tenemos nuestras reservas el de las listas de espera tanto en el contenido como en la actitud que ha tenido con este grupo

a todos efectivamente el tema de la medicina de precisión es un tema que puede abarcarse o plantearlo de una forma más general como voy a intentar hacerlo yo efectivamente como planteaba la señora blanco intentando

pero que nos llevaría quizás a romper ese acuerdo que tenemos hoy puesto que cada uno tenemos nuestros puntos de vista y para llegar a un acuerdo todos dejamos pelos en la gatera efectivamente el tema que nos trae hoy el señor barrio viene a consecuencia de una interpelación que le hizo al señor consejero en el que

la explicación que entendía el gobierno vasco de las actuaciones que debían hacer en lo que tiene que ver con medicina de precisión o también denominada medicina personalizada el grupo socialista defiende que el sistema sanitario busque su desarrollo en el futuro con la incorporación de una investigación innovación y novaciones tecnológicas que mejores o que suponga una oferta sanitaria puntera

todos compartimos o debiéramos compartir que lo primero es el interés público por encima de cualquier otro interés y desde luego en el tema sanitario no puede ser entendido de otra manera

para el ciudadano mejoras en el diagnóstico que puede ser más rápido y menos agresivos y por supuestos mejoras en el tratamiento tratamientos más específicos

hospitalarias por otra parte defendemos la mejora de la eficiencia del sistema sanitario porque permiten recuperar recursos de personal de camas y equipamiento para ofrecerlas a otras patologías y así

por tanto estamos hablando de reorganizar recursos y de reordenarlos

personalizada que permite a los ciudadanos desarrollar una mejor calidad de vida evitando la aparición de enfermedades

a un paciente que ya tiene una patología o que está diagnosticado sino también efectiva para el ciudadano sano la contraprestación

tenemos que hacer del sistema público de salud un sistema sostenible y hay que ver qué recursos tienen que invertirse en la medicina del futuro además de ser capaces de seguir respondiendo a las necesidades médicas del presente por eso nuestra enmienda la que planteaba el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista recogía la necesidad

tanto españoles como europeos al objeto de potenciar los resultados en materia de medicina de precisión obviamente quienes

han hablado de políticas de prevención de la investigación de la sostenibilidad del sistema que yo creo son conceptos

eh bildu había planteado en su momento una enmienda transaccional que nosotros entendíamos que no basta con investigar que desde luego hay que hacer y hay que potenciar y apoyar a nuestros investigadores e investigadoras y además creemos que esta investigación

compartimos como ya hemos dicho anteriormente que el ámbito debe ser amplio puesto que entendemos que el tema de la medicina tiene que contar con una colaboración global

recursos y compartimos conocimiento entendemos que ese es un tema complejo como planteaba la señora blanco en el que hay aristas si

pero el grupo socialista se alegra del acuerdo alcanzado y entendemos que el gobierno vasco seguirá trabajando en el tema nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

y parlamentarias egun on guztioi siempre un placer saludaros de nuevo nosotros vamos a apoyar la enmienda transaccional que todo el mundo afirmamos sobre la denominada medicina de precisión no lo íbamos a hacer nos íbamos a abstener os cuento brevemente por qué y me siento

uno de los problemas más importantes que tenemos en las políticas de salud

son los precios de los medicamentos como bien sabe el señor consejero y el señor lehendakari pero no solamente los precios que suben

sino la distancia que hay entre los precios de medicamento y los precios del coste de los medicamentos el último ejemplo lo tenemos con el medicamento de la hepatitis cien que como dicen varias editoriales

cuesta el proceso de producción ciento sesenta y cinco dólares y se ha vendido el último precio tratamiento completo a veintitrés mil euros si el consejero no me corrige

hace unas décadas los laboratorios de biología molecular identificaron que partes de la cara genética partes del genoma y del proteoma

no hablamos de las enfermedades genéticas propiamente dichas que ya tenemos más de diez enfermedades en cribado

prevenir para identificar para detectar diez enfermedades genéticas puras no nos referimos a eso nos referimos a parte del genoma que pueden predecir

fue una revolución no solamente para el cáncer sino para un conjunto algunas centenares de enfermedades llamadas también algunas de ellas enfermedades raras

se apresuraron a dos tareas como es normal el primero organizar el sistema de patentes de los nuevos descubrimientos siempre hubo autores que decían que eso de descubrir parte del adn de un paciente de una persona un medicamento nuevo hubo una discusión científica que no está cerrada pero se realizaron unas patentes para evitar la competencia en un mercado muy interesante en un mercado cautivo donde el cien por ciento de la población es susceptible de hacerse el mapa genético o parte del mapa genético y la siguiente estrategia dijeron

esto está caro hay que hablar con los médicos que son los que prescriben estas cuestiones

hay que hablar con los colegios profesionales hay que hablar con los medios de comunicación con los gobiernos con los parlamentarios y con los grupos políticos de la bondad de esta propuesta terapéutica y así se está haciendo en todo el mundo también en el congreso de los diputados

toda la población sobre todo quien pueda pagarlo los países ricos

y proponer las modificaciones genéticas oportunas para que estas no se den es muy atractivo esto se puede hacer en cada persona

o en los grupos vulnerables los últimos datos que he recogido anteayer mismo es que se empezaron a conocer precios precios de tratamientos completos no hacer solamente el mapa

como es lógico los gobiernos viendo estos precios los últimos precios que yo conozco son mayores todavía los gobiernos y los sistemas públicos de salud

francia como alemania como austria como los sistemas de sistema nacional de salud como el nuestro

es imposible decían unos es inasumible decían otros esto no es sostenible decían otros para los presupuestos públicos

arcas públicas sobre todo en las terapias genómicas de cáncer completas con terapias completas personalizadas como muy bien explica el parlamentario barrio

estamos a favor del progreso científico no tenemos más que darnos todos la enhorabuena de que las ciencias de la salud progresen y cada vez tengamos más elementos para combatir la enfermedad

y defendemos la oportunidad que las personas que lo necesiten tengan acceso a nuevas terapias

no tiene límite fundación roche incluida y deben calmarse y deben discurrir por vía éticas

los gobiernos deben negociar con firmeza con las multinacionales y establecer las alianzas oportunas entre los partidos políticos entre los gobiernos del ámbito europeo entre los que estemos en el mismo lado para obligar a modificar

por eso proponemos por unanimidad esta enmienda en donde tendremos tiempo para discutir con más profundidad y más despacio en el marco del plan oncológico integral de euskadi qué y cómo vamos a hacer

porque es bastante complicado cómo ajustar los intereses de nuestra población a los intereses de los consejos de administración

cual es la situación al menos en estados unidos y en parte de los países de europa se están destruyendo presupuestos públicos en base a que los consejos de administración ganen más ganen más y ganen más bienvenida sea la ciencia

sobre todo para algunas enfermedades que no tienen en este momento alternativa

investigan estas nuevas terapias no puede ser bienvenido

con estas propuestas para la mayoría de la población eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta desde el escaño con su permiso brevísimamente

y el no enmendante también a la enmienda de transacción yo creo que es importante también para agradecer al señor uria a la señora blanco las reflexiones críticas que han hecho sobre el tema efectivamente como estamos en una fase

es bueno ser conocedor también de los riesgos de las dudas de los temores de las desconfianzas que puede haber por eso mismo yo cuando me he referido en mi intervención inicial a esta política en relación con la medicina de precisión medicina personalizada me refería a cuestión de gobierno

de la defensa fundamentalmente de la salud pública porque detrás de los gobiernos estamos los ciudadanos están los ciudadanos no solamente los pacientes porque esta medicina ya se proyecta contra sobres y a favor del conjunto de los ciudadanos por eso mismo

ser capaces de impulsarla y hacerlo con conocimiento de dónde están los riesgos o las desconfianzas tenemos que hacerlo de esa manera estratégica que decíamos en el propio documento en la propio moción desde luego

todos en esta cámara creo que estamos del mismo lado en relación con ser conscientes de que hay peligros o de que hay riesgos pero todos también estamos del mismo lado para

revolucionaria dentro de la medicina muchas gracias eskerrik asko

egun on guztioi el motivo de la presentación de esta moción

y está funcionando peor desde que en dos mil trece se puso en marcha la planta de coque

desde entonces hasta esta fecha han sido múltiples las paradas de emergencia las paradas no programadas y las averías que han dado lugar a una

al vecindario a una afección incluso a la salud del vecindario que no había tenido en años anteriores fíjense

entre un funcionamiento normal de petronor es la foto de abajo y un funcionamiento como el que está teniendo en muchas de las ocasiones en los últimos meses y en los últimos años

donde se ve realmente cuál es el efecto de petronor cuando no

como digo no está funcionando bien en muchas ocasiones cuál sería cuál debería de ser la misión del gobierno en este caso en primer lugar saber cuáles son las causas qué está pasando saber por qué sucede

ocasiones repetitivos y en tercer lugar evaluar si este régimen de funcionamiento anómalo afecta negativamente tanto a la calidad del aire como a la salud de las personas que viven en el entorno de ahí

en lo referente a la autorización ambiental integrada y la calidad del aire y al departamento de salud o de sanidad

a las sustancias químicas que emite petronor tengo que decir que ha sido posible llegar a un acuerdo transaccional con

debido a que los grupos efectivamente han entendido que la situación no es normal y sin embargo no tengo la sensación de que hace quince días el gobierno hubiera entendido el mismo mensaje por un lado la consejera tapia vino a decir que el expediente de petronor está limpio sin una sola mancha vino a decir

el consejero arriola dijo que los límites legales se cumplen pero no dijo que se han eliminado una serie de controles durante los últimos años que hacen que sepamos menos sobre la actividad de petronor y el consejero darpón dijo que el departamento de salud cumple sus obligaciones dijo además el consejero darpón una cosa que de alguna manera me molesto y es que hablo de

de cáncer en la comarca teniendo en cuenta que si por algo me caracterizo es por no decir una sola afirmación sin traer una evidencia o un dato que lo corroboré y no me corresponde a mí decir

es igual en todos los municipios e incluso hay municipios como sestao o barakaldo que tienen unas tasas de envejecimiento mayores que las de los municipios que

y no tienen un quince por ciento más de cáncer de próstata pero no me voy a meter ahí porque

lo que más me preocupo de lo que usted dijo usted dijo una cosa tenemos que pensar

dijo usted y eso sí me preocupa me preocupa que lo diga un responsable de la sanidad pública de este país el mayor responsable porque

es que no volvamos al pastoreo pero la suya es la de proteger

la salud de las personas y claro si algo

o el cumplimiento de los límites legales que se establecen para el funcionamiento habitual no son los que tenemos que aplicar aquí tenemos que poner mucho más mimo porque

y si la diatriba tiene que ser entre elegir entre los impuestos que paga petronor o la salud de las personas como ya he oído

nos estamos equivocando de debate porque no son excluyentes y voy a leer un párrafo de un discurso

van unidos la responsabilidad medioambiental es palanca de transformación y competitividad como herramienta para ganar el futuro y ser una industria medioambiental y socialmente responsable esto lo dijo

él fue quien dijo que no se puede disociar una cuestión de la otra por lo tanto

que si queremos proteger a petronor si queremos proteger la actividad de petronor lo último que tenemos que hacer es reducir los controles medioambientales que le estamos aplicando

en todo el mundo han cerrado más de cincuenta refinerías y treinta de ellas han cerrado en europa europa no tiene petróleo apenas tiene petróleo y tiene que traer el petróleo de otras parte del mundo y hay que tener en cuenta de que cada petrolero que traemos

la otra no tiene valor es decir europa está en una situación de desventaja competitiva respecto a las refinerías del resto del mundo

el treinta por ciento de las refinerías que quedan en europa y eso

al futuro de petronor en los

doscientos millónes de euros doscientos millónes de euros y en los dos últimos años ha ganado doscientos millónes de euro también

pero es una ventaja circunstancial se ha aprovechado

pero petronor no es más competitiva a día de hoy de lo que era en dos mil catorce sus exportaciones han bajado el último año un seis por ciento eso significa que en el momento en que o la demanda interna disminuya

y qué vamos hacer entonces vamos a seguir reduciendo los controles medioambientales

y las refinerías rusas están puestas en la taiga donde no hay nadie pero la refinería de petronor es una refinería urbana que está puesta

y no se pueden reducir los controles medioambientales para asegurar su competitividad los expertos internacionales dicen que la competitividad de las refinerías va

reducir sus emisiones sus emisiones de ce o dos sus emisiones asociadas al cambio climático porque si no tendrán que ir a comprar los derechos de emisión al mercado libre

les va a introducir una incertidumbre que perjudica su competitividad y dos mejorar su eficiencia energética ser más eficientes en el uso de la energía bien todo eso va asociado a la sostenibilidad medioambiental si queremos que petronor sea competitiva lo que no podemos hacer es reducir el control sobre la refinería tenemos que buscar una refinería que sea más sostenible

y para eso es necesario incrementar el control por lo tanto tengo que decir para terminar que esa presunta dicotomía entre medioambiente

y voy a terminar con una cita que ya le

del tribunal europeo de derechos humanos que dijo que en aplicación del convenio europeo de derechos humanos la ciudadanía europea tiene derecho a disfrutar en su domicilio

y que los poderes públicos deben adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger este derecho pues bien estamos en europa

y a esa gente este gobierno le debe un compromiso un compromiso de controlar la actividad de petronor para que no tenga los perjuicios que está teniendo en los últimos años

me alegra que hayamos llegado a una moción de transacción donde se reconoce que efectivamente petronor no está funcionando bien y que lo que hay que hacer con petronor es controlarla mejor

sea más sostenible y más eficiente que en el fondo

gracias señora presidenta señores consejeros señorías buenos días señor becerra

frase de la justificación de su moción y dice todas las actividades industriales son susceptibles de provocar un impacto en su entorno

y podíamos decir todos los seres humanos somos susceptibles de desarrollar actividades antrópicas que puedan provocar impacto en nuestro entorno lo podemos decir

tenemos ejemplos varios y diversos está claro señor becerra que estas afirmaciones maximalistas no nos aportan mucho más allá de expandir una nube gris sobre cualquier actividad en este caso la actividad industrial y poner como digo la actividad industrial en el punto de mira de la sospecha siempre

en genérico y ha puesto la sospecha

yo creo que hay un consenso implícito interinstitucional social cultural sobre la coexistencia

el respeto al medioambiente y a la salud de las personas esta coexistencia es posible y además es deseable usted dice que no es posible

esto tiene que ser posible lo tenemos que hacer posible porque es necesario

y es que la industria también está interesada en esto y eso me costa y supongo que le consta a usted

quiera afectar al medio ambiente más bien al contrario

trabaja y mucho y mucho hemos avanzado por no afectar negativamente al medio ambiente

objetivo es compartido el de evitar el de reducir y

eliminar cualquier foco de contaminación derivada de las actividades industriales en conformidad con el principio que ya está establecido

paga y el principio de prevención de la contaminación que hablamos muy poco de la prevención de la contaminación y para todo esto tenemos tenemos unas herramientas importantes tenemos una legislación derivada de la legislación europea que es una de las más restrictivas

es lo que nos garantiza la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos a mí me sorprende cuando en una justificación de un folio

los efectos que tiene sobre la salud de los ciudadanos los riesgos para la salud de los ciudadanos y eso me demuestra que no hay argumentos técnicos sólidos para argumentar la moción porque no es así en todos los casos

derivamos esto en la salud de los ciudadanos

llamar a la salud de los ciudadanos es una llamada muy importante y eso o está muy justificado o solo sirve para alarmar y en algunos casos gratuitamente y creo que eso no nos corresponde y si me centro

en la moción que usted presentaba hablaba del plan de paradas y las paradas no programadas no tengo ni idea de esto y me he procurado informar

y efectivamente me dicen que usted planteaba

un riesgo que haya tantas paradas y yo le puedo decir hasta donde yo llego que todas aquellas paradas

programadas en el plan de inspección dentro de lo que constituye el mantenimiento preventivo planes rigurosos que se aplican

en todas las unidades y me voy a referir a las unidades de petronor si en estas inspecciones se detecta un desgaste o un posible fallo a futuro

reparación dicha parada se realiza bajo el procedimiento habitual de parada de la unidad estas paradas que no están dentro de los planes de inspección se incluyen en el epígrafe de no programadas yo

y me lo he creído porque sabe mucho más que yo usted tendrá algunos otros argumentos no lo sé en dos mil quince

me he metido en la página de petronor y he visto petronor

revisó la autorización ambiental integrada se regularon los límites de emisiones en periodos de arranque y parada y se controlan los límites en dichos periodos

para de forma parcial la refinería de muskiz e invierte cuarenta y dos millónes de euros en su revisión

hornos válvulas de seguridad máquinas instrumentación subestaciones eléctricas etcétera está programada cada cinco años

de euros en su revisión en cuanto al cumplimiento de la normativa en control de calidad del aire que también hacía usted referencia

puntos de su moción petronor dispone de cuatro cabinas de calidad del aire en el entorno y se controlan los parámetros

que están programados controlar en continuo de tal manera que es lo que marca la autorización ambiental integrada

de un número elevado de horas de unas cabinas móviles que se posicionan para medir la práctica totalidad de parámetros de los que existe tecnología disponible

no sé por qué dice usted que se han reducir estos controles porque son

más todas las cabinas móviles que se aplican durante horas

y luego nos hablaba también usted en la moción de la información

de los valores de los parámetros que se miden las cabinas fijas estos parámetros pasan por los técnicos de medio ambiente

y luego se publican o usted quiere publicar esos datos sin validarlos por los técnicos usted no se fía de los técnicos de medio ambiente o sí se fía de los técnicos de medio ambiente el no hacerlo esa validación podría provocar innecesarias en cuanto a los valores de las cabinas y la salud de las personas existe una red vasca de cabinas de calidad del aire y los peores valores en calidad del aire no están precisamente en las cabinas del entorno de petronor usted sabe qué cabinas

dan los mayores niveles de contaminación no son los del entorno de petronor

por lo tanto no podemos hablar como el foco de contaminación más grave

hay otros puntos que tienen peores datos por lo tanto

que tenemos en euskadi petronor no supera esa media creo que nos encontramos

nos movemos entorno a petronor en una red de control de la calidad del aire que es

y cuenta con las mejores tecnologías disponibles comparado con el resto de comunidades autónomas

es la mejor la que existe aquí en la comunidad autónoma y la tecnología más completa la que existe aquí por lo tanto

entiendo algunas de las afirmaciones que hace hoy mismo

ha parado la caldera de la planta tres y lo ha informado también en su página

que hoy jueves veintitrés se paraba porque va

en marzo del dos mil diecisiete petronor da por terminada la parada general una parada en la que se han invertido cuarenta y nueve millónes de euros de los que veintitrés se han destinado al mantenimientos específico de la propia parada y veintiséis millónes a inversiones

todo lo que ha incorporado nuevo dos mil diecisiete señor becerra usted dice que necesita

seis meses en marzo del dos mil diecisiete yo creo que también es transparente

web pero también tiene la mesa interinstitucional y también tiene el panel público de asesor donde se pueden incorporar los movimientos sociales del entorno para debatir los temas

interrogantes y que petronor les está informando por lo tanto que yo creo que es muy importante que hagamos la inspección y el control aplicar la legislación

una enmienda con dos puntos cumplimiento de la legislación porque tenemos la más exigente y si cumplimos la legislación que tenemos que es la más exigente tendremos
una herramienta muy potente y segundo punto inspección y control amaitzen joan

gracias y para eso tenemos otra herramienta en la comunidad autónoma que son los planes de inspección y control hemos tenido dos planes

de inspección y control y si hacemos eso correctamente seguramente que el departamento de salud no va a tener ningún trabajo solo validar lo que se está haciendo si cumplimos la ley y si hacemos bien los trabajos de inspección y control por lo tanto creo señor becerra que lo que tenemos que trabajar es porque se cumpla la ley y porque se haga la inspección y control no creo

quiera contaminarnos ni enfermarnos no creo no lo puedo creer

a compuestos orgánicos volátiles y a hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales para efectos crónicos se concluye que el es descartable para efectos distintos

lo que estamos diciendo es que no es descartable los efectos para el cáncer pero se decía más se decía más decía que en el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los metales

no se han considerado suficientes para realizar una adecuada caracterización de la exposición klaro gero zuek erdibidekoan etorri eta esaten baduzue

gracias presidenta y buenos días otra vez señor otero es que no sé si al final usted hace que todo lo que me preparo al final no pueda casi utilizarlo porque

en intentar responderle por empezar por el final porque

de pedir opinión siempre y cuando les interese y siempre y cuando el resultado sea lo que ustedes opinan porque no es verdad es que ya no sé si ustedes mezclan las cosas por desconocimiento o con intención

la mesa interinstitucional en la que participa el gobierno vasco con los tres departamentos implicados el de salud el de medio ambiente y el desarrollo económico junto con los ayuntamientos afectados o en los que la actividad de petronor les puede incidir

la mesa de seguimiento que es competencia municipal en la que participan los ayuntamientos implicados los vecinos y las organizaciones que se dedican al medio ambiente claro que se cuenta con los vecinos claro que damos importancia a la participación

usted pretende que en la mesa interinstitucional estén los vecinos y los colectivos ecologistas

es otra cosa entonces vamos a dejar que la competencia municipal haga lo que tiene que hacer

con los ayuntamientos pregunte a sus concejales qué pasa con la mesa de los ayuntamientos y con los colectivos ecologistas y dejemos al gobierno trabajar con los ayuntamientos entonces no mezclemos los dos ámbitos porque no es lo mismo y digo

por desconocimiento o por intentar enredar en el tema son dos ámbitos y dos participaciones diferentes así que de fobia nada respeto a la competencia municipal y usted dice

ya me explicará qué puntos quiere votar a favor porque después de su intervención no sé con qué está de acuerdo

carga veladamente contra la empresa veladamente carga contra el gobierno vasco y los tres departamentos y pretende

que eso que usted habla del benceno por ponerle un ejemplo no puede hacerlo al margen de la normativa europea porque por qué en petronor sí y una petrolera en glasgow no por qué en petronor sí

por qué usted sabe que estos temas son muy serios y que hay que atenerse a lo que marca la ley

no se pueden meter componentes ni límites que hoy no están tasados señor otero

y usted dice casualmente las cabinas que son de petronor dicen unas cosas y las cabinas del gobierno vasco dicen otra y usted sabe igual que yo y yo vengo aquí sin enseñarle ninguna foto porque todos conocemos petronor

sean de quien sean están conectadas con la red de calidad del aire del gobierno vasco no quiere decir que el gobierno vasco no sabe qué ocurre en las cabinas dependientes de petronor pero usted cree que el gobierno de vasco me da igual el vasco

permitiría que una empresa haga lo que usted veladamente dice que hace

cosas que no son verdad y siempre habla de los mismos ha faltado una palabra que seguramente la utilizará en su réplica

ya nos vamos conociendo todos el departamento de medio ambiente planificación territorial y vivienda que es

está comprometido en garantizar el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un

no tendrá ninguna duda además consideramos que el desarrollo sostenible es posible en euskadi buscando un equilibrio del que siempre hablamos

natural y tanta tasación tanto coto tanto

tanto mirar la ley cuando nos interesa en el párrafo que nos interesa ustedes proponen cosas que no son posibles traigan soluciones

qué quieren que hagamos hay control y transparencia porque está todo colgado y lo puede ver usted yo

hay transparencia en la página del gobierno vasco en todo lo que tiene que ver con calidad del aire

que el señor becerra nos proponía una redacción un poco más tajante que se mejore el tema de la calidad del aire si usted va al histórico es que se ha mejorado mucho

es que se ha mejorado mucho y luego nos decía la enmienda es que la enmienda que ustedes proponen no cambia nada

que es de las pocas enmiendas en el que no aparece el verbo continuaremos haciendo seguiremos mejorando que no le gusta a usted nada y lo puedo comprender porque dice el punto uno

la autorización minimizar el impacto extremar las medidas punto dos mejorar la configuración y optimizar el marco legal punto tres reforzar y colaborar para reducir punto cuatro reforzar la evaluación y mantener y el punto cinco que es el único que habla

entre la empresa petronor y el gobierno vasco en los tres departamentos implicados el punto seis era el que planteaba la señora lópez de ocariz que era un plan que el gobierno vasco por supuesto que va a hacer porque se termina y el punto siete era retomar y activar esa mesa interinstitucional de la que yo le he hablado a usted cuando la ha querido confundir con la mesa de seguimiento por tanto no diga que la enmienda no dice nada

le preocupan a eh bildu y a todos los demás y a los ciudadanos que no se puede venir aquí con alarmas sociales con este tipo de temas

interesada en que los ratios de contaminación del aire en que las partículas en lo que sale de las antorchas en todo eso salga en cumplimiento de la ley que lo que planteaba la señora lópez de ocariz del principio de quien contamina paga

pero ni petronor ni nadie es que no se puede venir aquí haciendo

siempre en contra del mismo tipo de empresas es que no se puede querer tener una ley ad hoc para determinadas empresas en euskadi pero que no le afecte a la empresa en navarra o en la rioja o en burgos es que no podemos estar todo el día señor otero

para luego pretender saltárnosla cuando la empresa de turno no nos gusta y no se puede decir que hay unas cabinas

porque son de petronor hay que desconfiar de ellas y que las del gobierno vasco dicen otras cosas cuando usted sabe perfectamente que están conectadas y que los datos están publicados

porque hoy con todo lo que hay en temas de transparencia con la exigencia ciudadana con las obligaciones legales y con las responsabilidades jurídicas nadie puede jugar a eso que usted dice que ocurre en euskadi

y si no traiga datos reales y no tantas fotos y no tantas gráficas porque es que como todo

y un nivel de cargas contra determinadas empresas y contra un gobierno vasco que está cumpliendo con la ley en la mano con todos los requisitos

pero con la ley según el artículo tal la empresa petronor está incumpliendo en esto

si no aparece en la normativa europea mire señor otero y lo peor de todo

lo único que se pretende es crear una alarma en una parte de la ciudadanía que son los tres ayuntamientos implicados por eso se creó esa mesa de seguimiento porque los alcaldes eran los primeros que querían que el pueblo participara de esas reuniones junto con los colectivos ecologistas que eh bildu se encargaba de recordarnos que tenían que participar en el diálogo la información y la transparencia

por eso por tanto creo que aquí hay que venir no sé en fin más allá de gráficas y fotos

pues un poco ya de criterio ya no sé si político técnico o cual pero es que

habla de cosas reales y luego termino señora presidenta señor becerra una cosa siempre nos pasa lo mismo cuando llegamos a acuerdos en primer lugar no creo que haya

y menos en este tema creo que colaboran y van de la mano y en este caso unido al departamento de salud y por otro lado

creo que el esfuerzo lo hemos hecho todos probablemente usted es uno de los que ha hecho el esfuerzo puesto que era el grupo proponente pero yo sinceramente no creo que desde luego el grupo socialista haya firmado la enmienda

desde luego por eso no la hemos firmado hemos firmado la enmienda primero porque entendemos que tiene que ser

implicados porque el gobierno participa trabaja y le interesa que el funcionamiento de petronor y de todas las empresas vascas vaya acorde a la ley pero desde luego si usted ha entendido que hemos firmado un acuerdo porque estamos acusando a petronor de hacerlo mal

sinceramente y por último pedir disculpas a los grupos porque la enmienda viene solo en castellano porque saben ustedes que ha habido premura a la hora de firmar

más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

tras su múltiple intervención el pasado día diecisiete era obvio

más creo yo más justificativa del trabajo que se tomó para preparar su omnipresencia en el pleno que porque se entienda necesaria

haber escuchado a tres consejeros explicándonos que aun tratándose de asuntos variados

entendían que básicamente se trataba de aplicar normativas las cuales en sus ámbitos las aplican técnicas y técnicos de la administración pública y cumplen normativas propias

los consejeros interpelados o preguntados nos explicaron que no dudan del buen hacer de sus técnicos lo cual usted ratifico

también espero que usted se ratifique esto que le voy a decir no lo dijeron ellos esto lo digo yo alguien cree que algún consejero o

es capaz de forzar el olvido de alguna medición de obviar algún control de permitir soslayadamente algún tipo de incorrecta función en la empresa y de esa manera permitir que contamine la zona poniendo en riesgo a sus pobladores si alguien piensa eso

entiendo que se respondió suficientemente el pasado día

por un lado reiterare que si nos ceñimos a lo debatido con la señora tapia

en la medida que nos referimos a paradas no programadas incidencias no previsibles se trata algo ajeno a la normativa de seguridad industrial que regula solo las inspecciones periódicas

a hacer esas paradas programadas luego el departamento agota sus competencias fiscalizadoras con esas paradas y sus medios personales y materiales

colaborar con petronor para reducir drásticamente las no programadas que es lo que pone

descuidando el objetivo prioritario solicitar el mantenimiento de la intensidad de inspecciones y reforzar la relación con la empresa es lo que parece lógico

para intentar entre todos alinear las paradas no programadas y por cierto a día de hoy el expediente

a título informativo le diré que desde el dos mil catorce petronor tiene un programa específico para reducir en lo posible las paradas no programadas y averías de unidades y parece que está consiguiendo reducir algo

y ya por otro lado y en lo que respecta a la parte que más preocupa a la ciudadanía como consecuencia de una acción contaminante que no es otra que la salud

se viene haciendo una evaluación de riesgos para la salud de la población derivada de la exposición tanto aguda como crónica a los contaminantes presentes en el aire siguiendo por cierto

esta evaluación de riesgo utiliza un método que combina información sobre toxicidad de contaminantes y las vías de exposición por las que alcanzan a las personas

de aparición de efectos adversos en quienes están expuestos en este método por cierto se utilizan los escenarios más desfavorables y se toman como referencia excesos de riesgo muy bajos

para de esa manera detectar problemas y tomar en su momento decisiones en este momento se ha valorado compuestos orgánicos volátiles en aire

y la evaluación de riesgos ha puesto de manifiesto que no es previsible encontrar efectos de cáncer por exposición

se observa un cierto efecto aplicando el modelo para el benceno en el que en cualquier caso los niveles de calidad del aire están debajo de los límites de inmisión exigibles en la normativa de la comunidad europea

los valores de riesgo tomados como referencia por eso se está vigilando específicamente

estos resultados buenos y con una técnica contrastada se tiene suficiente información porque

verá picos como el del benceno aquí picos de todo en casi todas las estaciones incluso

está limpio da picos en valderejo y en urkiola para el ozono pero lo da en el informe de salud pública de dos mil dieciséis

como le decía estos datos son buenos técnica contrastada y ya suponen una evaluación continua de los riesgos para la salud por ello solicitamos

no requiriéndose un protocolo específico nuevo e innovador y por eso pedimos una interconexión potente entre salud y medio ambiente porque los datos de medio ambiente son los que van a dar la referencia para que

propuestas hemos añadido en la transaccional otros temas que no me repito porque ya se los han dicho dicho esto explicadas técnicamente las razones por las que no se debería alarmar no puedo finalizar sin pararme a reflexionar que lo ocurrido el pasado pleno señor becerra

un cierto desconcierto en todo lo dicho una dispersión de ideas que generan a nada que nadie diseccione lo que se dijo una confusión sobre las pretensiones particulares

pero lo grueso que en principio así visto parece concreto en cuanto

lo componen elementos que resulta que son abstractos o inconcretos por ejemplo usted le preguntó al señor arriola y le explicó que le preocupaba

los sensores que más me preocupan que son los de unas sustancias que son btx benceno xileno tolueno acto seguido

se olvidó del btx y tras citarnos la práctica totalidad de los cánceres que existen en el mercado se centró en el cadmio cromo y arsénico por cierto

le puedo aclarar que si usted decía que el cadmio es cancerígeno probado de próstata esa agencia lo cita para pulmón y riñón

la atsdr lo cita para pulmón aunque en ningún caso habla la atsdr de cancerígenos probados no nos lleva mucho

pero se ve que el mundo de la ciencia no termina por ponerse de acuerdo en las patologías que pudieran provocar diferentes productos aunque también es muy cierto nunca hablan muy bien de estos productos

debería servir para exponer o debe de servir para exponer a nivel opinativo o ideológico cualquier posición cuando se trata de verter informaciones técnicas

debe hacerlo del modo más objetivo posible y con informaciones contrastadas de otro modo hacemos flaco favor como es decir que usted dijo

y tras afirmar que el arsénico contrastadamente produce una patología concreta

lógico pero es una lógica manipulada señor becerra

cuál es el umbral de concentración científicamente contrastada que pueda producir tal patología

ni las concentraciones absolutas de arsénico en su mapa ni el relativo porcentaje de cánceres en diferentes lugares ni otros agentes orgánicos inorgánicos o genéticos causantes de ese cáncer solo nos dijo que el arsénico es malo y eso ya lo sabíamos

si a todo ello le añado que a nada que uno se mete en internet a ver las variables de las diferentes estaciones que por euskadi hay

se ofrecen las mediciones de benceno tolueno y xileno pues hombre se ve

en general empieza a darse saque de un día cualquiera de la semana pasada las veinticuatro horas

tolueno y xileno se pueda sacar inmediatamente da la media horaria de lo que se ha producido de los vertidos en resumidas cuentas

está cumpliendo la normativa específica de los diferentes ámbitos a los que usted se refería lo cual no solo es razonable sino que es lo obvio que le corresponde hacer a una administración y toda esta obviedad

previamente no sé contaminación semántica en asuntos de este tipo hay que elevar en cierta medida el tono

de que se gestionen bien una serie de cosas forzar forzar sí que es lo que hace esta transacción que

sabiendo que las cosas se hacen bien pero si se pueden mejorar háganse pero nunca la exageración

y por otro porque la exageración derivada de un marasmo de datos

suficiente y entreverada con lógicas alarmistas lleva a innecesarias

pio baroja ya lo dijo la verdad no se puede exagerar

el resultado de esta moción porque dos de los grupos que firman la transacción dicen que no era necesaria y un grupo que no la firma coincide

si ustedes creían señor telleria señora lópez de ocariz que todo estaba bien

que habla de reforzar de mejorar de revisar de incrementar no la firmen tan sencillo como eso y claro

intenté que las dijera aquí en esta sede y se negaron a comparecer me hubiera gustado que vinieran

porque entre otras cosas la señora tapia dijo que no sabía qué estaba pasando en petronor

en petronor las cosas no están funcionando bien la única cuestión que le voy a enmendar a la señora rojo es

los parlamentarios la alarma la crean las llamaradas de veinte metros

eso es la alarma por eso estamos hablando esto aquí si petronor estuviera funcionando bien

si funciona bien si los controles se cumplen pero no está sucediendo eso y esta moción viene a reflejar eso que petronor no está funcionando bien

a decir cuáles son las razones los motivos las intenciones de petronor para que no funcione bien entiendo que tampoco quieren

pero le tengo que decir que las tendencias europeas a día de hoy son que para ser más eficientes las refinerías vayan a hacer una parada cada cuatro o cinco años

ha hecho solo en este año once paradas con ese régimen de funcionamiento no solamente es que contamine más es que no es eficiente es que no es competitiva petronor funcionando así no es competitiva y es lo único que he intentado

las interpelaciones y en las preguntas somos más inquisitivos y a veces sacamos datos bueno pues también el señor darpón me dijo una serie de cosas y pues lo entiendo dentro de la deportividad parlamentaria pues lógicamente

siga funcionando mal no solamente

es competitiva y tarde o temprano va a haber problemas y claro que la red de calidad del aire no está funcionando todo lo bien que debiera no está funcionando bien y por eso una de las cosas que hemos pedido es

ya lo ha dicho el señor otero es que cuando el pico empieza a subir nos ocultan los datos para hacer una validación manual y yo no creo que los técnicos de medioambiente

hagan cambios en esa validación lo que estamos pidiendo es que se proporcione a la gente los datos en tiempo real y si luego hay un error que lo cambien nadie va a decir nada lo que no puede decir es que seis meses después se intente entrar en las gráficas

seis meses después los datos no están con lo cual algo está funcionando mal y me alegro de que esta moción sirva para que mejore porque la moción

que esta cámara de alguna manera se pronuncie en relación a lo que he dicho que petronor no está funcionando bien y que queremos que funcione mejor y que queremos que haya un mayor control medioambiental

pero el minuto que me queda sí quiero hacer referencia a la competitividad de petronor y a una cuestión

usted señora lópez de ocariz su grupo ha promovido una rebaja fiscal brutal que ahora mismo

la influencia que tiene pero dentro de unos años posiblemente bien lo sabremos petronor paga setecientos millónes de euros de impuestos al año ustedes le van a rebajar posiblemente

y claro ha coincidido que han justificado esa rebaja de impuestos en que la recaudación va bien bien la recaudación va bien en buena medida porque empresas como petronor están teniendo dos años muy buenos

le vaya peor el agujero fiscal que nos van a crear ustedes con la reforma que acaban de hacer va a ser más que preocupante y me gustaría que quedara constancia de eso aquí porque tiene relación también con esto de que estamos hablando porque petronor no es solamente es medioambiente no solamente es salud también es impuestos
y también en eso ustedes lo están haciendo mal gracias eskerrik asko becerra jauna

señor becerra cuál era el objetivo de la moción porque me he perdido creo que el objeto de la moción y su intervención no han tenido nada que ver

lo que me lleva a pensar que está utilizando petronor para hacer política política municipal pues me parece bastante triste

algunos términos que ustedes han puesto aquí para hacer política municipal y nos decía que por qué firmamos la enmienda de transacción

nosotros queremos que se cumpla la legislación la legislación que como le he dicho tenemos

más restrictiva mundial porque nuestra legislación se deriva de la legislación europea y es la más restrictiva no sé si eso le vale igual no le vale a mí me vale y por lo tanto si hace

una revisión se la autorización no me parece mal que se vuelva a revisar no me parece mal por eso voy a apoyar ese punto y voy a apoyar por ejemplo que se refuerce la inspección le he dicho

e intensificar el control de inspección si es que los puntos que ustedes han puesto en la moción yo los puedo apoyar perfectamente porque

por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han firmado le decía antes que para el grupo popular el enfoque ambiental

para nada se acuerdan de la prevención de la contaminación empiezan

este producto o el otro que en fin me parece muy bien esas lecciones pero las prefiero en otro ámbito la plena aplicación de la normativa

y el pleno cumplimiento de las medidas correctoras que se establecen en la autorización de la actividad

todo el trabajo y el esfuerzo una de las herramientas como les decía antes que tenemos nosotros como comunidad autónoma es el plan

reforzar aquellas medidas que consideremos que son débiles y le decía antes los valores límites y el alto número de parámetros de control son con diferencia los más restrictivos del sector en el conjunto de las comunidades autónomas los que se dan aquí eso

no lo dice el gobierno vasco esto lo dicen otros informes que no ha hecho el gobierno vasco

al gobierno vasco creo que desde luego tiene que intensificar

estar vigilante que no creo que no esté creo que lo está haciendo ustedes piden un plus más me parece que sí se puede

creo que estos tenemos las mejores tecnologías del momento

ha actualizado su material la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones ha hecho inversiones

mejora de la fiabilidad de los equipos sustitución de cambiadores de calor y permuta de depósitos en materias más duraderos o materiales

hace seis meses por lo tanto creo que también está invirtiendo luego me va usted a la productividad oiga yo no sé igual quieren perder dinero

pero como dice usted pagan ochocientos millónes de media a la hacienda ochocientos millónes de euros anuales de media por lo tanto señor becerra creo que no nos hemos dispersado nada en la iniciativa usted sí porque luego tocaba la reforma fiscal pues mire eso lo dejamos para otro día no le importa

la legislación es la más restrictiva mundial y le voy a dar un solo dato ya que la señora rojo no hace más que pedirme datos sí

valor medio anual a no superar veinticinco microgramos por metro cúbico agencia de protección ambiental estados unidos

doce doce microgramos es un dato es una realidad parece que usted y ya dentro de europa

usted dice somos los campeones del mundo y ya está

este alguna cosa más señora rojo yo ya veo que

de buen rollo y cuando ve que hay cosas en las que discrepamos pues baja aquí

y ras ras le pega a todo y además tiene la de pedirme a mí los datos cuando usted no aporta ningún dato y yo precisamente lo que le enseño que usted lo desprecia me dice usted enseña fotografías y tal

de datos oficiales claro que la red de calidad del aire

esos son datos y son datos oficiales y son datos oficiales también que ustedes que tanto defienden

ni lo uno ni lo otro ni la defiendo ni la masacro

todo el mundo sabe que la externalización de los costes medioambientales da beneficios a las empresas entonces todo lo que puede externalizar lo externalizará y que este gobierno como todos está para controlar y para ser cada vez más exigentes evidentemente entonces a partir de ahí

yo le digo que la llave de las cabinas las únicas cabinas que miden los compuestos orgánicos volátiles de petronor las tiene petronor

pero ni que la gráfica hubiera yo pintado más datos en el año dos mil seis petronor emitió mil quinientos noventa toneladas de compuestos orgánicos volátiles en el año dos mil quince últimos datos disponibles

y está emitiendo cada vez más la trayectoria es ascendente con lo cual

a lo que hay que conseguir de participación y no participación nosotros lo que décimos es que lo que hay que conseguir es que haya un foro que esté liderado por el departamento de medio ambiente

y tenga participación social de los colectivos preocupados por lo que está pasando

y ustedes nos acusan de crear alarma que no que es al revés nosotros llevamos años trayendo este tema aquí no porque queramos crear alarma sino porque nos han alertado nos han alarmado y nos alarman los vecinos que todos los días están viendo y están viviendo y están sufriendo las consecuencias

las inspecciones hablando de transparencia de datos la inspección que se hizo en el dos mil catorce no es pública la que se hizo en el dos mil quince

y en la del dieciséis de problemas de aire también quiero decir que las pocas veces que se ha inspeccionado

da problemas y da incumplimientos en la autorización de la autorización ambiental integrada pero es que en el dos mil dieciséis se comprueba

consejero en noviembre nos contesta que se está a la espera de los resultados de lo que haya

ha habido mucha emisión de ruido ha habido mucha alarma por ruido

en fin yo lo voy a dejar aquí porque

diálogo entre sordos o diálogo de besugos cuando lo que estamos aportando desde hace años son datos de incumplimientos datos de emisiones datos de problemas y ustedes se empeñan

maravilloso maravilloso yo vamos a votar a favor del punto uno dos tres

la parte que se refiere a la salud no podemos estar de acuerdo y la parte que se refiere a la participación ciudadana tampoco podemos estar de acuerdo y evidentemente

y seguiremos intentando trasladar la alarma que ya está generada a este parlamento gracias eskerrik asko otero jauna

gracias presidenta mire señor otero yo de venir con el sable nada es que es mi carácter yo creo que ya me conocen todos aquí

entonces entenderá que si yo he acordado con cuatro grupos y con usted no pues no le voy a decir en el mismo tono al señor tellería que a usted porque además de creer que vengo con el sable usted pensaría que estoy chalada digo yo porque yo lo pensaría eh quiero decir si fuera el señor tellería diría

es que se trata de venir aquí y confrontar políticamente con ideas concretas respecto a lo que usted dice que le toca hablar antes que a mí y luego respeto a lo que digo yo y usted dice que

intenta que la persona que ha plasmado la firma en una enmienda pues intentar mantener un poco el diálogo cortés en el parlamento

mucho más que yo aunque mi tono parezca un poco más vehemente pero es que a mi edad

y mucho menos los manipulo yo no digo no le exijo a usted datos porque los traiga yo

los defiende los compara y los explica

nos enseña unas gráficas y unas fotos pero luego no es verdad o no es una verdad entera lo que usted dice y eso es lo que le he venido a decir por lo tanto no los enseño

pero una verdad al cien por ciento no medias verdades luego usted dice

en este caso estamos hablando de petronor y en otros momentos hemos hablado de otras cosas

es defender por un lado la legislación y el cumplimiento de la misma y por otro lado es no hacer demagogia con un tema serio que el tema serio sí es la alarma social

efectivamente no se crea de una manera gratuita pero sí se crea con afirmaciones que hacen determinados responsables políticos porque ustedes compartirán conmigo que no es lo mismo

que lo diga yo o que lo diga un ciudadano del pueblo porque la repercusión y la importancia que se le da a la afirmación

y por eso cuando determinados responsables políticos van a determinados municipios

alarma social y me dice el señor otero pero es que nosotros hemos hablado con los vecinos y nosotros pero qué se cree que en esos tres municipios solo hay ciudadanos de eh bildu o qué mire el ayuntamiento

y tenemos casas del pueblo y tenemos compañeros que viven en el municipio y con los que también hablamos porque como entenderá

por tanto aquí todos hablamos porque en esto sí que no es un diálogo de sordos hay una colaboración bidireccional entre los partidos políticos

o simplemente quieren compartir temas cuando se les convoca a una reunión y con esto qué le quiero decir señor otero que

creo que hay que tener mucho cuidado y le vuelvo a decir lo mismo usted cree que se está cumpliendo con la ley sí o no con la ley no con la ley que le gusta a usted

no con la que hay con los límites que pone la normativa europea se cumple sí o no

esa es nuestra obligación y luego ser ambiciosos que eso es otra cosa señor otero

puede ser creo que no y usted viene con el no antes de sentarse a negociar

muy clara y yo creo que se ha quedado un poco regular cuando ha visto que el señor becerra firmaba la enmienda eso es lo que creo que ha ocurrido

y de todo esto nos importa creo a todos a todos nos importa también a esos vecinos que usted quiere utilizarlos en este debate para decir

no queremos que participen y que no van a ser escuchados y le vuelvo a decir es mentira le vuelvo a explicar lo mismo el gobierno vasco tiene un foro que ya existe

interinstitucional y luego hay una mesa de seguimiento en la que están esos vecinos están los movimientos ecologistas está el ayuntamiento

que esa mesa de seguimiento tiene un orden del día que en función del tema que se trate cualquiera puede pedir la comparecencia de quien considere que puede aportar al debate que se va a suscitar ese día por tanto participación sí

una cosa son las instituciones y otra cosa es que ustedes que son el adalid de la participación quieran quitarle a los ayuntamientos la competencia que les corresponde en este caso que es la mesa de seguimiento por tanto aquí no se trata de grandes defensores de una empresa y de

porque no es verdad y ustedes tienen mucha costumbre de hablar en general

y ustedes son los de los oligopolios pues mire señor otero si le ha parecido que he salido con el sable ya lo siento es que es mi carácter y esto es lo que hay y creo que mientras me vea aquí esto es lo que va a haber

simplemente por aclarar por aclarar si

o por otro lado le hemos dicho al gobierno que bueno que está haciéndolo bien y que probablemente si puede refuerce algo las cosas

plan de inspección y aparte de incluir la mesa interinstitucional para

más trascendentes de petronor que es el medio ambiente y su vinculación con la salud

entienda el parlamento vasco insta al departamento de salud a mantener y si fuera necesario reforzar

a que continúen manteniendo intercambio de información esto es lo que hemos aprobado hoy es decirle al gobierno no lo está haciendo mal y en la medida que pueda

podemos entendemos que esta iniciativa es una oportunidad para ocuparnos ya que es algo que es obvio que nos preocupa a todas de la situación de las personas pensionistas y en el día de hoy en concreto en relación al derecho subjetivo a la garantía de ingresos las personas mayores son unos de los principales grupos de población en euskadi debido en buena parte

actualmente casi un veinte por ciento de las personas que viven en euskadi tienen más de sesenta y cinco años es una realidad

en elkarrekin podemos apostamos porque en euskadi se desarrolle al máximo

y que no solo atienda a situaciones extremas sino que se adelante a ellas con elementos de prevención y promoción

garantiza protección y bienestar a sus ciudadanas y siempre teniendo muy en cuenta las que puedan generar mayores vulnerabilidades en este caso desde luego que los ingresos económicos son un elemento fundamental porque lamentablemente un número importante de personas mayores pensionistas a pesar de tener ingresos propios no pueden resolver su vida cotidiana con dignidad y holgura

y se encuentran por lo tanto en una situación de vulnerabilidad

sabemos también que el espacio para hablar de ello es la ponencia de autogobierno y así lo haremos desde nuestro grupo en este sentido y en los distintos espacios en los que tenemos representación

para revertir esta situación profundamente injusta desde la estructura pero eso

sabemos que esta prestación no es una solución a un problema estructural porque no va a las causas pero también sabemos que a día de hoy está siendo un instrumento que sin duda contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas que acceden a ella

y es por ello que a la hora de mejorar respecto a las personas pensionistas tenemos que defenderla también como venimos diciendo a lo largo de estos meses repensarla en una clave de fortalecimiento y avance

todas las que lo necesitan nos consta que hay personas pensionistas con derecho a esta prestación que no están pudiendo ejercer ese derecho y sabemos que al menos hay dos motivos por los que no lo hacen hay uno que tiene que ver con la falta de información con el hecho de no conocer que pueden ejercer este derecho que no lo tienen otro y que no podemos dejar de nombrar hoy

algunas voluntades sobre las personas perceptoras de la prestación hay personas pensionistas sin conocimiento y con derecho otras con derecho y conocimiento

no es la primera vez que manifestamos en este espacio nuestra preocupación por los discursos de corte xenófobo y estigmatizador de la pobreza

que tendría derecho pero siente vergüenza de pedir ayuda pero también sabemos que esto hoy no es el tema pero bueno no podíamos

en cualquiera de los casos celebramos el acuerdo que firmamos hoy porque a través de él vamos a impulsar medidas para que las personas pensionistas tengan un conocimiento accesible y veraz sobre un derecho de todas y todos en este sentido

que como ya se aprobó en marzo de este año realizar una campaña de comunicación en torno al derecho a la garantía de ingresos y que también suponemos que con la proposición del partido popular sobre personas que trabajan como autónomas se volverá a incidir sobre este tema

de contenido a esa campaña de comunicación que planteábamos dotarlo de contenido además tomando como referencia una de las proposiciones que nos han hecho distintos colectivos que han ido pasando a manifestar sus aportaciones sobre la reforma

por último simplemente un par de apuntes que nos parece importante destacar en relación al contenido del acuerdo y a la campaña que se realice el enfoque de género porque el perfil de mujer mayor pensionistas es uno de los más importantes ocupan un espacio de mayor representación dentro de las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos tenemos que tener en cuenta

a ellas además de esto queremos destacar también la consideración de la accesibilidad

por la vía de las nuevas tecnologías y consideramos que esto podría ser un riesgo de cara

diana de esta campaña entendemos que la accesibilidad también como acceso a la información de toda la población es un enriquecimiento que aportamos a este debate de hoy

muchas gracias señora presidenta en primer lugar anunciar que retiramos nuestra enmienda porque estamos de acuerdo con la transaccional a la que se ha llegado y yo por matizar algunas cosas de las que se han dicho aquí el sistema de seguridad social

ahí sí tenemos competencia exclusiva y es un sistema que

acordamos algunos hace ya muchos años y lo hemos ido mejorando y no es para complementar pensiones no es para complementar salarios no es para complementar paros es para que cualquier persona que no tenga esos ingresos suficientes

que puede servir para complementar pensiones puede servir para complementar pensiones entonces

de pensiones propio porque a lo mejor si lo tuviéramos hoy el que usted quiere

que no sé de dónde los íbamos a sacar para pagar la rgi

pero resulta que son las más altas de toda españa y el otro día en madrid alguien preguntaba por qué los vascos tienen las pensiones más altas y nadie se contestaba diciendo a lo mejor es que han cotizado más

pero de todo lo que usted ha dicho sí tiene razón en una cosa que tampoco sé por qué

de viudas que son las que tienen la pensión baja

no significa que tenga derecho a la renta de garantía de ingresos porque puede tener otros ingresos puede tener un patrimonio

nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento y conocemos el problema de muchas personas mayores que les da vergüenza pero les da vergüenza pedirlo porque tienen una cultura que hoy no se estila hoy estamos en la cultura de los derechos aquí todo el mundo tiene derechos y obligaciones no tiene nadie esta gente

hoy no lo hace aquí hay dos problemas unos porque no lo saben y otros porque a lo mejor

y cuando hablamos de esta campaña yo sí espero que el gobierno cuando la haga

y como le decía como estamos de acuerdo en el fondo como estamos de acuerdo en el planteamiento para esas personas porque sabemos que es un hecho real nosotros hace ya

planteamos que en la renta de garantía de ingresos hay dos colectivos claramente definidos los que están en el mercado laboral y los que no están en el mercado laboral

y a las que no están en el mercado laboral y no lo van a estar nunca no tienen ningún sentido que cumplan todos los requisitos que exigimos a todo el mundo

que como estamos todos de acuerdo se dice que sea con el mayor amplio consenso posible pues a ver si dentro de ese mayor amplio consenso posible somos capaces de diferenciar las ayudas

de aquellas otras que están en el mercado laboral y evidentemente tienen que cumplir muchas más obligaciones y requisitos para recibir la solidaridad de todos

insertos en el mercado laboral que es de lo que se trata en este caso y a lo mejor sí conseguimos diferenciar esos dos grupos de personas pues sería todo más fácil y más sencillo

repito no me voy a extender mucho más estamos de acuerdo con la enmienda

transaccional y por lo tanto votaremos a favor eskerrik asko damborenea jauna

sí gracias presidenta hoy hemos conseguido en esta iniciativa un amplio consenso de todos los grupos políticos y hay que felicitarse por ello saben que la pasada legislatura conseguimos que a pesar de todas las trabas que se quisieron poner

acabara compensando a los afectados por el medicamentazo con rentas bajas y seguimos insistiendo para que el derecho

no solo se ampliara sino que se informara a la ciudadanía de esa posibilidad en estas fechas hemos visto ese esfuerzo por parte del departamento de salud y también con el derecho a la vivienda larga e intensamente trabajado que está ahora en fase transitoria ofreciendo un techo a familias que no disponían de él al departamento

no le basta con que ya se hayan podido acoger cerca de un millar de familias sino que hace unos meses se

que a pesar de reunir los requisitos para reclamar sus derechos ejecutado los socialistas no nos conformamos con reclamar y legislar nuestros derechos queremos que sean efectivos y como hemos acordado no se trata

se trata de que los colectivos tengan además información suficiente para que su derecho sea efectivo un esfuerzo de claridad que es especialmente necesario

y las posibilidades que le ofrece la tecnología estamos inmersos en estos momentos en un proceso

de garantía de ingresos que partió el treinta y uno de mayo con la presentación del documento diagnóstico de la reforma

consejera la señora artolazabal en estos momentos estamos llevando a cabo todas las comparecencias para presentar aportaciones

con el que contaremos previsiblemente dentro del año dos mil dieciocho pero hay que destacar que están accediendo al sistema de garantía de ingresos no solamente personas que no cuentan con rentas de trabajo cuando se ha interrumpido su vida laboral sino que también acceden al mismo

para que les permita llegar a una vida digna nuestra prioridad ha de ser que todo ciudadano o ciudadana vascos reciban

la cual les permita satisfacer sus necesidades vitales tenemos establecido un sistema a través del complemento de las pensiones mediante la renta de garantía de ingresos

esa vida digna el gobierno vasco realiza un gran esfuerzo en el complemento de pensiones bajas a través de la percepción de la renta de garantía de ingresos pero está claro que las cifras nos demuestran que hay muchas pensiones que no llegan a ese mínimo y los pensionistas afectados no solicitan el abono del complemento a través de la renta de garantía de ingresos eso puede ser debido a que tienen otras rentas

a que los afectados no conocen que cuentan con esa posibilidad esa es la razón de la enmienda transaccional que hemos

y es por lo que se insta por parte del parlamento vasco al gobierno a que dentro del marco de la comunicación que se va a realizar una vez que alcancemos

consolidación y mejora del sistema de garantía de ingresos desarrolle una actuación dentro de la misma específica para dar la información necesaria para materializar el derecho de las personas pensionistas que tienen a contemplar sus bajas pensiones mediante

esta actuación específica incorporará también la perspectiva de género

de una manera diferenciada las dificultades de acceso a la información de mujeres con bajas pensiones y además contará con herramientas de comunicación concretas adecuadas que lleguen de una forma efectiva a estos pensionistas

de la reforma de la renta de garantía de ingresos y una vez concluida estamos de acuerdo que es importante llevar a cabo esta campaña de comunicación todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que es importante conseguir este

sistema fundamental para la cohesión la justicia

es importante que las personas puedan vivir con dignidad cuando se interrumpe su vida laboral cuando los salarios aun trabajando son bajos o cuando se jubilan

percibiendo a través del mismo pensiones dignas y suficientes debiendo de ser el sistema viable y sostenible ya que si la cuantía de esas pensiones son suficientes

de ingresos para poder llegar a ese nivel digno en el dos mil trece el partido popular impulsó un sistema sin consenso que ha cambiado la intersección de las pensiones del ipc a un nuevo índice que las mantiene prácticamente congeladas desde entonces

el partido socialistas aumentó las pensiones un treinta por ciento un cincuenta por ciento pensiones mínimas y un noventa por ciento

desde el dos mil once el partido popular apenas ha subido el uno por ciento en el dos mil diecisiete nueve millónes de pensionistas van a perder

momento de la inflación y si se cumple el objetivo de inflación del banco central europeo del dos por ciento en diez años nuestros pensionistas pueden perder un quince

por eso los socialistas hemos defendido en el congreso volver a vincular la subida de las pensiones al ipc

vertebral de la solidaridad intergeneracional y es necesario revertir la reforma de la seguridad social del partido popular

el índice de revalorización de pensiones está provocando pérdidas de poder adquisitivo a los actuales pensionistas así como el factor de sostenibilidad

reducciones importantes de las cuantías de las futuras pensiones de jubilación por eso una de las prioridades ha de ser la revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el derecho a percibir prestaciones y pensiones suficientes que garanticen un nivel

para ello es necesario aumentar los ingresos en el sistema comenzar por proteger empleo y su mayor calidad para mejorar la recaudación de la seguridad social pero si los ingresos percibidos por esos pensionistas no son suficientes

con la posibilidad de completar la cuantía de la pensión percibida

es más su necesidad puede ser aún mayor en los próximos años si no cambiamos la situación actual de las pensiones

es importante que los pensionistas conozcan esta posibilidad y el procedimiento a seguir para que puedan hacer uso de ese derecho en caso de necesidad es por ello por lo que vamos a apoyar la enmienda transaccional

el partido socialista con el grupo nacionalista vasco con elkarrekin podemos y con eh bildu y que aunque no ha firmado
también va a votar a favor el partido popular nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez

peticiones muy similares solicitando campañas de publicidad potentes para dar a conocer los requisitos de acceso a las ayudas de la ley de garantía de ingresos y la inclusión social

que sea el momento adecuado no vemos la necesidad de una campaña de publicidad ahora cuando estamos inmersos en una modificación y mejora del sistema es mucho más lógico y responsable realizar dicha campaña una vez modificada la norma es importante

pero con las novedades que se puedan presentar lo contrario nos parecería incluso actuar de forma irresponsable el hacerlo ahora sabiendo producir una modificación respecto al fondo del asunto como bien dice la proponente a pesar de que las

las instituciones vascas se han ocupado y preocupado por la situación de las personas pensionistas

y la muestra es que la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social contempla la posibilidad de complementarlas estas pensiones bajas con la renta de garantía de ingresos y esta decisión se tomó en el dos mil ocho por amplia mayoría

de las competencias propias no como y lo ha explicado el señor damborenea no me voy a extender en esto beraz

tiene sentido y razón de ser una actuación específica para este colectivo dada su especial vulnerabilidad

empleabilidad hemos hablado en varias ocasiones incluso de un itinerario diferente o específico para este colectivo para el acceso

ahora que estamos en plena revisión de la normativa reguladora de la renta de garantía de ingresos y de la mejora de la gestión de lanbide puede ser el momento de tener en cuenta la situación concreta del colectivo de pensionistas que complementan sus bajas pensiones por medio de la rgi eta amaitzeko behin ere lortutako

con respecto a las posiciones de cada grupo en relación al

en este parlamento y seguramente continuaremos discutiéndolas

no son para discutirlas hoy y estoy con usted en que realmente hoy lo que estamos es de acuerdo en el fondo de lo que se planteaba

nosotras también compartimos la importancia de una campaña individualizada la verdad es y también compartimos esta perspectiva de que informe correctamente tanto de derechos como de obligaciones por supuesto pero la iniciativa no era o no se refería a una campaña indiscriminada porque la iniciativa está enmarcada

en el complemento que ofrece la rgi a las personas con pensiones bajas y la rgi tiene un marco muy concreto

tiene un marco muy concreto unas condiciones concretas que nosotras la verdad es que esperamos que en el marco de la reforma puedan variarse para que algunas personas que en este momento quedan fuera

en este momento tiene un marco muy concreto y es en el que nosotras planteábamos esta enmienda no una cosa indiscriminada dirigida a cualquier persona ni sin tener en cuenta su patrimonio ni nada de lo que planteábamos y efectivamente sí que es verdad que tenemos

que en el resto del estado pero también tenemos muchas personas que en este momento están cobrando pensiones muy bajas por las razones que sean pero que están cobrando pensiones muy bajas

como esta comunidad ha hecho una apuesta por el sistema de protección social

de unas herramientas para poder dignificar esas pensiones que son bajas y para que esas personas puedan vivir en condiciones de vida dignas y de calidad y

aprovechar al máximo esa herramienta esa herramienta que es un derecho subjetivo es un derecho subjetivo no es una ayuda ni como nosotras queramos llamarlo

egin naiz dos cositas señora arregi completamente de acuerdo con lo que ha dicho respeto a los momentos para abordar este tipo

también es verdad que la necesidad de información no es de ayer por la mañana y que esto se podría haber abordado también en el pasado y no se ha hecho y señor damborenea ya lo siento pero he tenido que salir porque si no

el partido popular como el partido socialista han hecho con el sistema público de pensiones la gente vive cada vez peor y dado que podemos hacerlo lo mejor será buscar una solución de lo que esté en nuestras manos que esperemos que desde luego sea transitoria pero que desde luego no deje en la estacada a nadie tampoco a las personas pensionistas lo que ha comentado respecto a la posibilidad de realizar una campaña individualizada puede ser un elemento

también es interesante que a la gente se les recuerden sus obligaciones pero en este caso lo que estamos hablando es

sus derechos porque muchas de ellas ni siquiera las conocen pero también porque me consta que las personas perceptoras sus obligaciones las tienen bastante claras porque ahí está lanbide sistemáticamente

sin embargo en su discurso ha soltado usted una pátina de vergüenza sobre una persona que es perceptora de prestaciones sociales que no solo no comparto si no que es que además esas son las actitudes que dan cancha a la estigmatización de las personas empobrecidas nosotras como parlamentarias como miembros de grupos políticos tenemos

de ser coherentes y de cuidar nuestros discursos pero también tenemos la responsabilidad como parlamentarias en euskadi de prestigiar este derecho que ha sido un derecho que ha costado

ni una querencia de unas personas determinadas es una obligación porque así lo determina la normativa

tenemos que defenderla y protegerla a nadie le da vergüenza ir al médico este más enferma o esté menos pero sí

tener ejercido su derecho a la garantía de ingresos y me parece señor damborenea irresponsable porque que transformar eso tenemos que acabar con la criminalización de la pobreza tenemos que implicarnos todas también usted tenemos que implicarnos todas las personas en acabar con la pobreza no escondiendo a las personas en situación de pobreza sino luchando
y por ellas para transformar la situación y salir adelante sin dejarnos a nadie por el camino besterik ez mila esker eskerrik asko guanche andrea

la verdad es que no esperaba intervenir en el segundo turno pero parece que algunos se quedan así verdad intranquilos si no se les reparte un poco

no se entera o no quiere enterarse pero le voy a explicar una cosa este derecho lo hemos creado nosotros no ustedes recién llegados a esta cámara

de nada nosotros y los socialistas y el partido nacionalista vasco sí señora

nosotros ustedes no cómo me puede decir que hoy se vive peor que antes pero qué me está diciendo en qué país vive con quién vive usted

usted a lo mejor es que no sabe cómo se vivía antes y cuando habla de vergüenza será que no conoce usted a las personas mayores de este país será que no las conoce y sabe qué le digo que

no me voy a molestar en explicarle cómo son las personas mayores de este país especialmente las señoras mayores de este país si usted no lo conoce salga a la calle y apréndalo

señora sánchez yo no he venido a hablarle de las pensiones pero es que por lo visto

a ver le voy a decir tres cositas muy fáciles a ver si se le queda alguna el partido socialista obrero español es el único partido que congeló las pensiones

le voy a decir una segunda el partido socialista obrero español le pedía a mariano rajoy que pidiera el rescate en europa

el treinta por ciento tercera el partido socialista obrero español quería que las pensiones siguieran referenciadas al ipc

siento comunicarle que el señor rajoy es más listo que eso y además está a favor de los pensionistas y por eso hoy los pensionistas españoles
siguen cobrando la pensión eskerrik asko damborenea jauna

era perfectamente previsible pero es que yo le he dado los datos antes en mi primera intervención nosotros subimos

un treinta por ciento las pensiones en general un cincuenta por ciento las más bajas y un noventa por ciento

y ustedes desde el dos mil once a aquí han subido un uno por ciento y cuánto poder adquisitivo se ha producido si lo acabo de decir también y cuánto se va a producir los próximos años con la inflación

el sistema que se establecido ahora mismo entonces de qué estamos hablando de que ustedes son los únicos que han bajado ustedes lo que hacen ahora es hacer la bajada de las pensiones también en diferido se hace con la pérdida del poder adquisitivo que se va a ir produciendo en los diferentes años los pensionistas van a ir siendo cada vez más pobres sin que le haga ninguna bajada porque van a perder ese poder adquisitivo

no le suben porque prácticamente están congeladas están subiendo el uno por ciento y cada vez pierden más poder adquisitivo quién está

más subida ustedes con el sistema que han establecido con lo cual no me venga a dar lecciones porque evidentemente los números son los que hablan de la diferencia lógicamente hoy estamos en la enmienda transaccional hoy estamos en que es necesario la realización de esa campaña porque si esa cuantía de las pensiones que reciben los pensionistas vascos no llega

al que hemos hecho referencia los distintos grupos parlamentarios lógicamente

vasco de garantía de ingresos tenemos la posibilidad de poder tener ese colchón para que esas pensiones

aquellas que no lleguen a ese mínimo de dignidad que estamos marcando esa posibilidad y por tanto como se ha visto en los números

también hemos dicho que esa diferencia se puede producir por otra serie de cuestiones que no tengan derechos porque tienen otros ingresos

no lo pedirán porque no tienen información suficiente y no saben como hemos dicho en nuestras exposiciones

la realización de esta campaña una vez que lleguemos al acuerdo de reforma del sistema de la renta de garantía de ingresos que lo deseable será que sea con el mayor consenso posible dado la importancia que este sistema tiene para toda la ciudadanía vasca en ese momento se hará esa campaña de información para que llegue a mucha más gente ese

lo pueda ejercer nada más y muchas gracias eskerrik asko

la verdad que parecía que estábamos en un debate del congreso de los diputados

de las mismas quién recortó más si el partido socialista obrero español si el partido popular si las pensiones son suficientes o insuficiente

en el acuerdo alcanzado que menos mal que había acuerdo y que va a ser aprobado por

por lo tanto centrándonos en el debate de hoy alegrarnos de que esas pensiones más bajas en euskadi y dentro de las competencias que tenemos

más concretamente nos quedamos con esa campaña de publicidad que una vez que acordada dicha reforma y mejora de la ley

si es que no tienen conocimiento de la misma puedan conocer sus derechos y obligaciones y alegrarnos del acuerdo alcanzado besterik ez mila esker eskerrik asko